lehen aipatu dudan bezala y precisamente porque sostenemos dicha posición creemos que es necesario

se posicione ante lo que nosotros calificamos como disparate liberticida de un gobierno el del partido popular que retuerce las leyes y estrangula la democracia para protegerse de esta vez sí una mayoría silenciosa a la que pretenden amordazar para convertirla en mayoría silenciada poco podemos esperar en definitiva de un gobierno que deja en manos de una persona

por citar solo un ejemplo señalaba lo siguiente en el diario la gaceta

aunque a veces no lo queramos ver o escuchar tengo la íntima convicción de que dios está muy presente en el congreso

el partido popular las invoca las cortes son el órgano legislativo del estado y de dios el gran legislador del universo esa persona

es quien decide llevar adelante leyes como la ley de seguridad ciudadana toda una garantía en un sistema democrático vamos si quitáramos o sustituyéramos la palabra

o yihadista pero para no caer en un éxtasis mariano como el que podría invocar seguir con las palabras

voy a cambiar en una iglesia

eso sí es cierto pero estaba pensando en todos los que no están como decía y solo así

que ve como primero le roban los derechos laborales sociales económicos y humanos y ahora

y sí me podrán decir que son mayoría en el congreso de los diputados que tienen una holgada mayoría absoluta

así lo quisieron y es cierto pero no podrán negar que se encuentran en la más absoluta soledad que no hay prácticamente ninguna formación política que respalde

su liberticidio de derechos con leyes como esta y probablemente no perciban el rechazo casi unánime que esta ley provoca en la ciudadanía

podría acordarme ahora de las veces que en esta tribuna desde su formación política se ha utilizado el ejemplo de hitler como un ejemplo de ascenso por la vía de las urnas al poder para luego llevar a cabo políticas absolutamente demenciales y en este caso contrarias

porque para euskal herria bildu es evidente que esta ley no es otra cosa que el parapeto defensivo de un gobierno cada vez más denostado y cada vez más solo y ante una situación excepcional de descontento social puedo ir más lento porque tengo mucho más y la veo ahí apuntando

que ha de darse es la de romper con su voluntad de hacer del estado español un estado de excepción

esta vez del conjunto del estado español porque en euskal herria

la venimos soportando desde hace décadas no en vano

un laboratorio un escenario para poner en práctica imaginarios y tácticas

la seguridad y la estabilidad de quienes se encuentran en la parte

y sí diré una cosa esta iniciativa va dirigida principal y fundamentalmente contra los causantes de este destrozo democrático que es partido popular y sí nos gustaría también que tenga una lectura en euskadi

desde luego no tenga que pivotar por elementos tan capciosos y tan peligrosos como los que señala esta ley pero para hacer ese camino también hay que hacerlo con los hechos y que hoy se detenga a tres jóvenes en algorta por pegar unos carteles con la foto de arkaitz bellón

ez dugu ahaztuko ni siquiera ez dugu barkatuko ez dugu ahaztuko no nos parece que sea la mejor manera de romper con una lógica que va a cercenar derechos y libertades

aquí y en el estado español la democracia la libertad les estorba

a la marginación y a la exclusión no sería en todo caso mejor garantizar la seguridad humana la de todos y todas en lugar de dar cobertura y seguridad a aquellos que están depauperando y depreciando la seguridad humana y la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía tal vez lo que esté diciendo les esté pareciendo duro o excesivo incluso exagerado

ni mucho más bruto que lo que han podido decir

problemática autoritaria camino a una dictadura amenaza a la democracia choques entre austeridad neoliberal y democracia popular o efecto de domesticación a largo plazo esos han sido algunos de los calificativos que ha merecido la ley de seguridad ciudadana del señor fernández díaz en

yo creo que solo eso les tendría que hacer reflexionar pero aún con todo no son originales esta ley es una ley que sigue el camino

después del párrafo anterior que sigue la agenda de leyes

esa ley hablaba de la necesidad de dotar de carácter punitivo a las ofensas orales y escritas a la unidad de la patria la bandera o el ejercito

pues habla de las ofensas ultrajes a españa a las comunidades autónomas a los símbolos signos o emblemas ya ve casi una transposición literal de una ley que se aprobó en mil novecientos seis pero hay más también evoca de manera lamentable a otra ley como la de la represión de la masonería del comunismo de mil novecientos cuarenta en la que decía que toda propaganda que siembre ideas disolventes contra la religión la patria

será castigada con la supresión de periódicos o entidades que la patrocinasen

y nos encontramos nuevamente con otra que también parece

menor cuantía económica a la hora de ser castigadas pero habla de las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a la patria a las instituciones públicas autoridades agentes

y también nos evoca a otra ley de un fausto recuerdo la de mil novecientos setenta de vagos y maleantes

que imponía sanciones punibles para quien alteraran el orden y el decoro del régimen y también entre las grandes novedades de esta ley encontramos

que evoca directamente a esa en definitiva esta ley es una

ustedes son capaces de empeorar aquello que parece que no puede ser peor y lo hacen además en un contexto en el que ni siquiera tienen la coartada de la existencia a la violencia terrorista que es lo que utilizó

para justificar la existencia de esa intromisión en los aspectos fundamentales de la libertad como el derecho a la privacidad y a la intimidad

señora llanos este gobierno va a conseguir que una serie como cuéntame que hasta hace poco la veíamos todos como retrospectiva parezca futurista y que lo que en esa serie vemos que es

que todavía hoy vivimos bajo el dominio de su gobierno y de sus instituciones por que esta ley no solo

sobre la persecución de la prostitución podríamos hablar también de su lectura sobre la persecución del consumo de drogas no ya del tráfico de drogas también del consumo de drogas también de la marihuana

de reencuentro con dios como decía el señor fernández díaz pero desde luego dando la espalda a la sociedad él en la entrevista

señalaba que llevaba muchos años dándole la espalda a dios hasta que en las vegas se reencontró con él no sé si vía aparición o vía invocación o a través de las cabinas

y elvis pero lo que sí sé es que para abrazar a dios a dado la espalda a la ciudadanía y me parece absolutamente peligroso y no simplemente un juego de palabras porque yo creo que define muy bien

que aterroriza que realmente tiene más que ver con los capítulos iniciales del cuéntame que con lo que ustedes dicen que tiene que ser un país avanzado

esta ley no busca proteger a la ciudadanía sino protegerse ustedes de la ciudadanía y para eso manejan conceptos tan peligrosos como el de la violencia legalmente punible así

que las policías rompan cabezas para disolver de forma indiscriminada una manifestación como en valladolid hace escasos cuatro días coincidiendo con su convención nacional

parece un elemento altamente peligroso para la estabilidad y el orden social del estado debía ser y sin embargo sí les parece

zuek lege honekin gehiegikeri polizialak babesten dituzue les dan la posibilidad a los agentes de la policía a los agentes de la autoridad de que

y casi de privilegio casi de fuerza mayor sobre el resto de pruebas

y así los señalan por ejemplo cuando hablan de los escraches

y que para ustedes eran poco menos que una alteración del orden público nuevamente y una manera de coartar o de intimidar los derechos

ustedes son más peligrosos que los jueces que todavía se atreven a intentar impartir justicia por eso probablemente algunos

laburbilduz eta amaitzen joateko esta ley se ajusta a la perfección a lo que en cierta ocasión señaló un escritor español

él decía que la dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer y la democracia se presenta desnuda porque ha de convencer esta ley blinda al poder y bunqueriza a sus instituciones

a una mayoría social ciertamente desarmada pero profundamente cargada de razón e indignada porque es necesario que no venzan que no destrocen la vida y el derecho a una vida que merezca la pena de ser vivida es necesario y es urgente parar esta espiral represiva y retrógrada y es necesario y urgente en primer lugar echar primero atrás este anteproyecto de ley

después su gobierno y después su régimen esa es la lógica

llevarse para conseguir una sociedad pacífica y una sociedad realmente democrática y creo ademá que es bueno para todos nosotros y nosotras y

creo que es bueno que esta ley se echara para atrás incluso para ustedes porque parece

y si me permiten les voy a señalar un pasaje de su historia de la historia del estado español que tendría que hacerles reflexionar

en mil setecientos setenta y seis el diez de marzo a una persona cuando la sociedad española estaba atravesando una hambruna brutal

se le ocurrió lanzar un edicto que decía lo siguiente quiero y mando que toda la gente civil y sus domésticos y criados que no traigan libres de las que se usan usen precisamente de capa corta

de forma que de ningún modo vayan embozados ni oculten el rostro esto es el edicto que hizo gregorio de esquilache y que tuvo lugar al motín de esquilache no

nuestra enmienda de totalidad es lo suficientemente clara como para que aquellos parlamentarios que la hayan leído entiendan perfectamente cuál es la posición de upyd nosotros en esta enmienda de totalidad mostramos total rechazo al anteproyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana porque atenta contra los derechos civiles y democráticos reconocidos y protegidos

de los ciudadanos y proponemos pedir al gobierno de españa que retire el anteproyecto de ley por innecesario y porque existen suficientes instrumentos para garantizar la seguridad y los derechos civiles y democráticos de la ciudadanía lo cierto es que todo el mundo está en contra de este anteproyecto de ley básicamente todo el mundo

del partido popular han alzado sus voces los sectores más variopintos de la sociedad actual desde los sindicatos de la policía hasta movimientos sociales como el quince mil pasando por juristas todos los partidos políticos de la oposición al gobierno del partido popular todo el mundo por lo tanto salvo el gobierno del partido popular está en contra

una interpretación amplia del concepto de seguridad pública y considera que esta puede ser puesta en peligro por las manifestaciones pacificas de descontento social de lo cual deducimos que lo que se pretende es

silenciar el descontento social a través de una ley y esto evidentemente nos parece una muy mala idea incluso

inconstitucional lo cierto es que primero recortan derechos y han recortado muchos derechos en estos últimos dos años y ahora pretenden recortar

parece que el objetivo fuera hacer o convertir a la sociedad española en una sociedad civil más temerosa

la pregunta por lo tanto entre otras muchas es teniendo en cuenta los graves problemas que tiene el país

el gobierno del partido popular se centra en este tipo de asuntos y crea un problema nuevo donde no lo hay esta es la cuestión y

el proyecto que pretenden en relación a la ley del aborto lo mismo donde no hay ningún tipo de problema

en lugar de resolver los muchos que hay lo que hace es dedicarse a crear nuevos problemas bastantes problemas tiene que resolver este gobierno como para entender que se dedique a esto en lugar

los principales problemas del país y creo que son evidentes cuáles son como para que admitamos que el gobierno del pp se centre ahora

tiene un plan de empleo juvenil solicitado por la unión europea que no termina de poner en marcha tiene un plan contra la pobreza solicitado por el congreso de los diputados que lo tiene guardado

tiene una ley de custodia compartida pendiente y solicitada por el congreso que tampoco termina de ponerse en marcha graves problemas que en lugar de resolver

sino que como digo se dedican a crear nuevos es lo que

que se dedique a lo importante rescatar a los ciudadanos de la crisis sin recortes sociales justo lo contrario de lo que está haciendo

de la población considera la seguridad ciudadana como el primer problema actualmente existente en españa menos del dos por ciento

el principal problema del país o el trece coma cinco por ciento que considera que es la corrupción o el fraude estos son los principales problemas del país señores del partido popular

luchen contra el fraude fiscal luchen contra la corrupción política esos son los principales problemas que tienen los ciudadanos en lugar de crear nuevos problemas es una ley esencialmente sancionadora tanto cuantitativa como cualitativamente la ley

de ley restringe pretende restringir el ejercicio de derechos fundamentales en particular los derechos de reunión y manifestación

el derecho de huelga y omite toda norma de garantía del ciudadano a la administración se propone el aumento de las infracciones y el agravamiento

se plantea una desproporción de las sanciones las sanciones se agravan en su cuantía y se aumentan los plazos de prescripción de las mismas siendo incluso más graves en el caso de las multas que algunas penas impuestas a las faltas que el nuevo código penal pretende destipificar

judicial se propone una hipertrofia del preventivismo se plantea una persecución de formas de protesta ciudadana pacífica se plantea y se propone la persecución del ejercicio de derechos fundamentales no entendemos cómo el gobierno del partido popular se puede meter

el anteproyecto por lo tanto en nuestra opinión es un anteproyecto innecesario tal como se presenta y atendiendo al espíritu que lo invade es

y viene a crear problemas allí donde no los hay el gobierno ya tiene instrumentos suficientes para garantizar la seguridad ciudadana nos parece

inconstitucionales el anteproyecto de ley saca del código penal determinadas acciones ilegales y las convierte en meras faltas administrativas esto

de las normas es en realidad un recorte de garantías ya que el acusado no tendrá derecho a la tutela judicial efectiva es decir será el gobierno el que sancione y no un juez tras un proceso conforme

lo que el gobierno de españa debe hacer es garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y no solamente su protección y con esta ley esa seguridad jurídica

habló en una comparecencia que hubo en el congreso de los diputados

lo que hay que proteger no son los sentimientos colectivos sino individuales de los ciudadanos esto es lo que debe protegerse en fin todos estos son nuestros argumentos y algunos más para haber planteado nuestra enmienda de totalidad que como digo es lo suficientemente clara y será la que finalmente votemos rechazo

consideramos que atenta contra los derechos civiles y democráticos y porque supone un claro recorte de las garantías de los ciudadanos es un anteproyecto

este anteproyecto ya que actualmente existen suficientes instrumentos para garantizar la seguridad y los derechos civiles y democráticos de la ciudadanía

a luchar contra el paro a rescatar a los ciudadanos de la crisis a luchar contra la corrupción política a luchar contra el fraude fiscal estos son los principales problemas del país por todo esto votaremos nuestra enmienda de totalidad hay una transaccional firmada por varios grupos nosotros no vamos a apoyar esa transaccional que además transaccional firmada por eh bildu

formación que ha promovido la vulneración de derechos y la seguridad ciudadana durante los últimos años tanto en euskadi como en el resto de españa por lo tanto por coherencia

gracias presidenta buenas tardes señorías efectivamente

opinen no no le gusta es más si me apuran no le gusta

por si acaso eso de entrada no es otra cosa que soberbia yo estoy en posesión de la verdad

y punto redondo y la soberbia es lo que tiene señorías que da vergüenza da vergüenza ajena pero además la soberbia en el ejercicio del poder no solamente es vergonzante sino que además es muy pero que muy peligrosa

en esta cámara está todo el mundo de acuerdo y lo cierto es que el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que aprobó el gobierno

de la policía del consejo fiscal según un informe emitido ayer de los operadores jurídicos de todas las asociaciones

es un anteproyecto de una ley represora que intenta amordazar a la ciudadanía y no permite ejercer sus derechos civiles

de reunión o de manifestación es una ley que pretende impedir la movilización de la ciudadanía acabar con la presencia de la gente en la calle y abortar ahora sí en este supuesto abortar la protesta cívica

y las cosas no pasan porque sí pasan en la medida en que dejemos que pasen la derecha siempre se ha caracterizado por querer imponer el orden y digo el orden que no la seguridad

y se ponga tranquilamente y como pedro por su casa a reivindicar derechos a exigir trabajo educación justicia ayudas a la dependencia

gobernación en mil novecientos setenta y seis y ahora en el dos mil catorce lo dicen de nuevo

y lo dicen porque creen firmemente en ello porque creen en el orden público aunque le llamen seguridad ciudadana pero no hay ninguna duda

todos sabemos de qué es de lo que hablan hablan de ese concepto jurídico indeterminado predemocrático y propio de una dictadura todos sabemos lo que traen los conceptos jurídicos

cámara legislativa todos los conceptos jurídicos indeterminados en manos de la derecha y en manos del poder en general traen lo de siempre arbitrariedad y abusos de poder el fiscal llera que ahora es consejero

siempre ha diferenciado entre lo que es orden público y lo que es seguridad ciudadana son dos conceptos muy distintos tan diferentes que incluso podríamos afirmar

entre un estado autoritario y un estado democrático y como digo y lo que pasa es que el gobierno no hace lo que debe hacer sino todo lo contrario y además lo hace con soberbia en los momentos de crisis como los que estamos viviendo en los momentos de

de los momentos incredulidad increencia en la política

un gobierno que se precie para mejorar la situación de los ciudadanos es legislar

legislar para atajar la injusticia no para reprimir aquellos que protestan contra ella lo que procede en realidad es avanzar por el camino de unas mayores garantías

y libertades fundamentales no avanzar en la manera

lo que nos hacen es colar de rondón un amparo normativo de más medios y medidas represoras unas multas inconcebibles desaforadas

en un país en el que con la que está cayendo la ciudadanía ha demostrado con creces su mayoría de edad democrática y donde la conflictividad como han dicho otros

mínima incluso donde la propia policía dice que esta ley es necesaria

aunque todos los estados democráticos están obligados a mantener unos niveles aceptables de seguridad para que sea posible el ejercicio de esos derechos y libertades individuales las acciones de esos gobiernos tienen que estar dirigidas a garantizar la seguridad pero han de tener

constitucional un diáfano respeto constitucional unos presupuestos y unos límites definidos

que lo primero es que nunca podrán vulnerar el contenido esencial de los derechos fundamentales y libertades publicas de los ciudadanos reconocidos por

para el ejercicio de los derechos y libertades pero nunca la seguridad es un fin en sí misma hay que decir además que las potestades

y concreción por ley porque sino de otra manera estaríamos abriendo las puertas a la arbitrariedad su efectividad no puede defender de la interpretación que haga la administración de esos conceptos jurídicos indeterminados que tanto conocemos como razones de orden público

han servido para limitar derechos desde esas claves esenciales propias de cualquier sistema democrático de cualquier estado de derecho la propuesta que se ha hecho de modificación de la ley de seguridad ciudadana

nos coloca a nosotros a los ciudadanos en la más absoluta inseguridad jurídica supone una regresión histórica más propia de un

avanzada y sobre todo porque la reforma lo que trata

y simplemente es de impedir manifestaciones y protestas contra esas decisiones del gobierno que son las que han provocado el aumento de la inseguridad

de los ciudadanos ante la justicia ante la salud ante la educación que han provocado fundamentalmente lo que se puede llamar inseguridad vital les hablaré de ello luego esta ley atenta frontalmente contra la democracia esta ley no es para la seguridad es para contener amarrar y amordazar a una ciudadanía que cada día recortados sus derechos y nos toca y es lo que toca impedirlo y esta y no otra es la razón de esa enmienda transaccional que hemos firmado exigiendo al gobierno que retire la ley

para que en la medida de sus competencias

quien tiene que garantizar la seguridad ciudadana y con ese planteamiento del gobierno de trabajar para las personas permita que los ciudadanos vascos

y libertades hemos exigido

seguridad ciudadana lo que hay que hacer es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas eso significa garantizar los servicios públicos garantizar la educación la sanidad y sobre todo lo más importante la seguridad vital yo les emplazo señorías a que se lean una ponencia muy interesante

el verano del año pasado en la universidad complutense hablando de la seguridad vital entre otras cosas

de los ciudadanos se lo recomiendo si vamos por ahí avanzaremos no no sé si avanzaremos pero por lo menos lograremos de momento parar esta insensatez y seguir

lo que nos interesa que son las libertades y los derechos de los ciudadanos de este país gracias eskerrik asko gallastegui andrea

como se ha comentado por las personas que me han precedido en el uso de la palabra este anteproyecto nace mal mesedez isiltasuna ya que

y rechazado hoy por esta cámara también lo ha sido por todos los grupos del congreso de los diputados a excepción del grupo popular y también por colectivos como amnistía internacional

la federación de periodistas de españa el foro judicial la comisión española

y de la legislación de extranjería e incluso por la asociación unificada de la guardia civil entre otros recientemente la institución euskadi a las juntas generales de álava más concretamente el veintidós de enero se aprobó también una enmienda transaccional de rechazo a este anteproyecto entre todos los grupos junteros a excepción del grupo popular

ha servido también de guía a la hora de llegar en esta cámara a la enmienda transaccional que se presenta al parlamento a la cámara y sin querer entrar en un análisis exhaustivo del articulado del anteproyecto explicaremos las razones principales de nuestro rechazo

cercana al antiguo orden público y esto es algo que nos preocupa se basa en un concepto expansivo de la seguridad ciudadana inasumible desde nuestro punto de vista en términos constitucionales

a coartar libertades fundamentales de expresión y participación

del ejercicio de cualquiera de los derechos y libertades entendemos nosotros que la seguridad solo es justificable en tanto en cuanto justifica todas las demás libertades y las hace posible no podemos tratar

en segundo lugar la reforma incide especialmente en el régimen sancionador

administrativo sancionador la persecución de ciertas conductas sociales reprochables sustrayéndolas al ámbito de la jurisdicción penal sustrayéndolas al poder judicial con las consecuencias

parece concebido como una especie de código penal administrativo de la seguridad de hecho de los cincuenta y cinco artículos que contiene el texto veintisiete están dedicados al régimen sancionador

proteger la seguridad ciudadana sino más bien perseguir o disuadir toda clase de conductas que puedan ser molestas o incómodas para el gobierno

acumulando tipos procedentes de la anterior ley en concreto catorce tipos junto con otros procedentes de la despenalización de conductas once y otros más de nuevo cuño treinta y dos de los cincuenta y siete tipos que se recogen esto son todos de nuevo cuño y parece que recogen una casuística

contra las políticas del gobierno español el anteproyecto tipifica como hemos dicho cincuenta y siete infracciones casi el doble que la actual ley orgánica de protección de seguridad ciudadana vigente desde mil novecientos noventa y dos entre muy graves graves y leves

conceptos jurídicos indeterminados que permiten una gran discrecionalidad a la hora de calificar una conducta si es ilícita o no por la autoridad gubernativa

de libertades públicas como las libertades de expresión de circulación

por otro lado también entendemos que el anteproyecto no mejora sustancialmente la ley vigente de mil novecientos noventa y dos en lo que atañe a la seguridad jurídica

al no establecerse un régimen de garantías ni para los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad al no regularse con claridad los presupuestos habilitantes de las intervenciones policiales

de todos los ciudadanos y ciudadanas como hemos dicho antes en este anteproyecto se sustrae de la jurisdicción penal y de sus garantías el enjuiciamiento de conductas supuestamente atentatorias contra los intereses generales para atribuírselo a las autoridades administrativas de seguridad encargadas en su prevención que se constituyen en alguna ocasión en juez y parte y con el importante matiz de que las sanciones económicas que se pueden imponer conforme al anteproyecto para infracciones graves hasta treinta mil euros

con lo cual compartimos lo manifestado por el consejo de estado en su dictamen sobre la reforma penal vinculada a este anteproyecto

que la sustracción de la jurisdicción penal del enjuiciamiento de estas conductas acarrea una minoración de garantías procesales para el ciudadano y de su derecho a la tutela judicial efectiva

por otro lado se elimina también en el anteproyecto la participación que actualmente tienen las administraciones locales las entidades locales en la prevención

mientras que por el contrario se permite específicamente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado puedan intervenir y denunciar con respecto a incumplimientos de la normativa local y finalmente resulta ambigua no sabemos si intencionadamente o no

y potestades de las autoridades de comunidades autónomas como euskadi que ostentan las competencias generales y ordinarias en materia de seguridad ciudadana sin perjuicio de las atribuciones reservadas a la administración estatal conforme a nuestro estatuto de autonomía la competencia ordinaria en la materia de seguridad ciudadana

resultando en tal medida la competencia de las autoridades estatales limitada a los supuestos en materias explícitamente contemplados en el propio estatuto de autonomía en concreto

de extranjería de las armas y de los explosivos no se trata por tanto de una competencia de atribución

malinterpretarse del texto también entendemos inaceptable desde el punto de vista competencial la pretensión de que las fuerzas de seguridad estatales queden habilitadas para denunciar infracciones administrativas a la normativa autonómica entendemos que esta interpretación pues chocaría de frente con

es conveniente que el texto no deje lugar a duda a este respecto por todas estas razones expresamos nuestro rechazo al citado anteproyecto y no obstante en el caso de que se considere importante y prioritaria su aprobación

de tramitación lo que plantea nuestro grupo como siempre es que hay que trabajar para mejorar sustancialmente el texto presentado y salvar las carencias que presenta actualmente que como vemos

gracias señora presidenta buenas tardes a todos sometemos aquí a debate y votación una propuesta que

precisamente por esto porque hay que hacer aunque sea una rápida precisión de técnica legislativa ya que en la exposición de motivos se expresa

lo que aprobó es el anteproyecto y como pues una muestra más de esa política que tanto está gustando tanto en esta cámara como en otras de esa estrategia de política preventiva de oponerse a todo de ni tan siquiera esperar a que se inicien los trámites legislativos ya nos oponemos

se puedan hacer aportaciones se aporten los informes preceptivos no directamente

siquiera vea la luz ese anteproyecto y aquí se ha hablado

si tiene muchos frentes el gobierno del partido popular y de la pérdida de tiempo

determinados temas que sí son de esta cámara los quiere llevar

este tema que es competencia del gobierno de españa competencia

y allí es donde se tiene que debatir y aprobar sin embargo aquí estamos debatiendo sobre el mismo eso

ustedes como les decía manifiestan un estado de ansiedad permanente que les lleva como decía a que la normativa legislativa siquiera pueda empezar la tramitación

los instrumentos normativos claro que sí pero para mejorar y acordar es necesario que se inicie el trámite sino difícilmente esta y estamos asistiendo a una oposición continua a iniciativas nacidas de la legitimidad sí

de votos obtenidos en las elecciones generales y esas iniciativas absolutamente legítimas ustedes no quieren que tengan el mínimo recorrido legislativo

al gobierno del partido popular y hay que detenerlo antes de las próximas elecciones eso es vamos no detenerlo a través de las urnas no sino de cualquier manera pero nosotros creemos en la democracia en nuestras instituciones en el parlamentarismo y por lo tanto en la necesidad de que este anteproyecto tenga el recorrido parlamentario necesario

aportar y en su caso mejorar simplemente

que las iniciativas que emanan de quién ha sido elegido por la ciudadanía aunque teniendo en cuenta el bagaje democrático de quien ha propuesto hoy aquí esta iniciativa y utilizando un símil cinematográfico es misión imposible y entrando en el texto normativo

reconocidos y amparados por todas las constituciones democráticas la seguridad ciudadana se configura como uno de los determinantes y como uno de los parámetros fundamentales

la seguridad ciudadana no puede desligarse de la seguridad pública entendiendo ambas como la actividad dirigida a la protección de las personas y bienes y como garantes de la convivencia pacífica

de justicia la seguridad ciudadana igual no es el primer problema señor maneiro pero sí es una demanda ciudadana

debemos abordarlos aunque no sea la demanda prioritaria desde una perspectiva integral

sustentado entre tres pilares fundamentales un ordenamiento jurídico adecuado

eficaces en la prevención y persecución de las infracciones entendemos que se hace necesario abordar una reforma

ciudadana es imprescindible mejorar la anterior normativa pero es que ustedes que tanto demandan que se oiga la cámara esto fue

de un grupo parlamentario que presentó una iniciativa en el congreso de los diputados para que fuera modificada la ley de seguridad ciudadana se hace necesario evitar intervenciones desde luego arbitrarias abusivas y discrecionales del poder público que encuentran justificación y cobertura en definiciones genéricas del concepto de seguridad ciudadanas y en supuestos

el objetivo del gobierno en armonía con el tribunal constitucional debe ser el de conciliar

y seguridad porque debe existir una ponderación de ambos conceptos las limitaciones admisibles

amparados por el principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el interés general la tramitación de los derechos conlleva inexorablemente el defecto de otros y todos ellos son conceptos que una sociedad madura deben convivir de forma armónica

españa es una democracia avanzada regida por el imperio de la ley y señor matute no serán ustedes quienes vayan a cuestionar y poner en solfa nuestro estado de derecho

para dar lección alguna sobre lo que deben ser los principios y valores que debe de presidir cualquier sistema democrático escuchar en boca del grupo proponente defensas a ultranzas de derechos fundamentales como la libertad de expresión

no nos parece un ejercicio como he dicho esta mañana de cinismo de cinismo ideológico propio de quien sigue sin condenar la vulneración del principal derecho fundamental del derecho a la vida

en españa los derechos fundamentales se encuentran constitucionalmente reconocidos y protegidos y aquí que se ha hablado de represión

una media de ciento veinte diarias y las fuerzas del orden intervinieron en trescientos ocasiones

por ciento del total euskadi es la segunda comunidad autónoma donde se celebra un mayor número de ellas con casi cuatro mil es decir una media de dos manifestaciones al día fíjense la represión que existe

señor matute cree realmente usted que tanto le gusta hablar de otros regímenes políticos que la incidencia cubana podría realizar tres mil manifestaciones al año solicitando de esos sí presos

la pregunta se responde por sí misma yo entiendo que el grupo proponente se oponga al futuro texto legal y lo entiendo porque rechazan todo aquello que suponga acotar espacios de impunidad para el libre ejercicio de la violencia y entiendo porque no tienen el más mínimo respeto de la convivencia pacifica en los espacios públicos lo entiendo

el mismo también impide que la calle pueda convertirse en espacios de exhibición colectiva para sus aquelarres propagandísticos

y lo entiendo porque el texto del anteproyecto va a impedir que los lugares públicos sean utilizados como campos de batalla para la práctica de ejercicios de guerrilla

que aquí hoy se ha dicho que en determinados contextos estaban justificados

que viniendo de quien vienen producen una gran indignación usted habla en la exposición de motivos de la ley de patada en la boca y al leer dicha expresión me he acordado de una imagen

que fue literalmente apaleado por sus antecesores políticos en el año noventa y tres por ser un cipayo y un torturador durante la celebración de las fiestas

seguro que en ese momento usted podía condenar esa agresión hoy la puede seguir condenando con la misma contundencia ustedes

cuestionan los parámetros democráticos de la reforma y quiero decirle como ya he transmitido en otras ocasiones que sus cuestionamientos la mejor garantía y el mejor refrendo para continuar con la misma yo después me referiré a la enmienda porque es verdad que la enmienda no tiene desperdicio y en algunos de los supuestos ya lo diré señora gallastegi usted ha hecho una soflamas partidista que yo entiendo

devenir que en este momento tiene el grupo

ver quién es más atractivo pero le diré

que sigue su trámite y que lo del consejo fiscal no es cierto no es cierto

en el tema de las manifestaciones se muestra favorable y señor

suena a frase demagógica que de las que tanto le gusta a usted pero no no es eso

para el conjunto de la ciudadanía y apostamos por una sociedad más segura para poder ejercitar nuestros derechos

con el interés colectivo la reforma es necesaria conveniente y oportuna como diré más tarde es una reforma ponderada equilibrada proporcionada y demandada socialmente termino expresando que en una democracia moderna y en un estado de derecho

eskerrik asko presidente andrea señora llanos la primera parte de su intervención iba casi a conseguir que yo pasara por encima de esta réplica y en todo caso le dedicara únicamente una frase de aldous huxley un escritor británico que decía algo así que cuando más siniestros son los deseos de un político más pomposo en general es la retórica con la que envuelve su lenguaje la primera parte de su intervención ha sido eso una retórica para intentar justificar lo injustificable

y tiempo nos dará en estos minutos que tengo que son menos que los que marca el reloj creo para poder responderle me había alegrado al ver todos estos pero creo que no no tres tampoco

yo creo que el motivo principal lo explica muy bien su propio anteproyecto no hace falta que usted

el anteproyecto habla del criterio de oportunidad y dice lo siguiente el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta legislatura la suya la del gobierno del partido popular nos encontramos en el momento adecuado para impulsar una ley que permitirá que queden mejor afianzados

públicos y demás ustedes lo que realmente tienen es miedo a la calle porque la calle se les está revelando y ese no es un problema que meta en esta cámara eh bildu ese no es un problema

que en las calles del estado español están diciendo que ya basta que el miedo tiene que cambiar de bando y que ya cuando pierden todo pierden también el miedo

en sus urnas de cristal en sus beneficios y favores en sus sobres en sus saltos a los consejos de administración les preocupa muy poco lo que diga la calle pero la calle les está clamando no nosotros para que no sigan por ese camino

claro cómo no pues tendría que saber que las mujeres de blanco que así se llaman esas de las que usted habla se manifiestan tantas veces como quieren

tiene todas las posibilidades del mundo para salir del país y para poder decir pero le diré una cosa para que la tenga clara su gobierno va camino de hacer realidad lo que fue

encierra a otro ministro con once perros para que acaben con él pero

de los aquelarres usted habla de las banderas y usted habla de las exaltaciones yo quiero ver

celebren un triunfo deportivo de su gloriosa selección

entiendo que contrarios a esta ley que deriva de la constitución magna algo tendrán que hacer pero usted y yo sabemos que no van a hacer nada que van a permitir

están defendiendo sus intereses los de los suyos aunque ahora les hayan salido un poco esquivos

formaciones políticas diferentes nos habla de la legitimidad de eh bildu y nos señala

hombre siquiera como interesados principales nos afecta cuando ustedes y su virrey delegado del gobierno decide que hay que suspender manifestaciones nos la suspende a nosotros

cuando decide que no se pueden hacer más manifestaciones como las de el once de enero lo deciden ustedes

que no cambia la circunstancia lo que denota y lo que evidencia es una falta de carácter democrático se ponga como se ponga y le moleste lo que le moleste que se lo diga yo o que se lo diga

ustedes temen a la democracia son refractarios a la democracia porque viven instalados en el recuerdo de las bellas épocas de la dictadura como ya señalaba jaime mayor oreja sí y ustedes saben mucho de cerrar periódicos también y ustedes se alegran y se jactan del cierre de egin

pero en cualquier caso no voy a perder mucho más tiempo porque me preocupa muy poco la consideración que ustedes tengan lo que no van a poder impedir porque yo he hablado de la ley de patada en la puerta no de patada en la boca que parecería por tal y como lo ha entendido que sería ley patada en la oreja

que no van a poder amordazar a la sociedad y no van a poder amordazarnos hoy tampoco aquí en este debate por mucha retórica porque ustedes en este anteproyecto lo que pretenden es acabar

el cumplimiento de la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales estos son los desahucios

esta es una de las razones que motiva esta ley pero ustedes dicen más cosas ustedes dicen que es una infracción grave también la participación el alteraciones de la seguridad ciudadana usando capuchas cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro impidiendo y dificultando la identificación

pero en cualquier caso ustedes dicen más todavía cuando temen que rodeen el congreso lo que se les ocurre es señalar como infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana

el senado o asambleas legislativas este es el verdadero espíritu de su ley una ley que quiere protegerles de la ciudadanía y lo que tendría que pensar porque yo no he dicho

yo quiero que ustedes salgan del gobierno y quiero que el régimen que ustedes defienden se acabe eso sí eso sí lo quiero

yo creo que este país se va a saber sobreponer a la pérdida inmensa que supone que unión progreso y democracia no apoye esta enmienda

que aguanten que este país ha salido de cuestiones más difíciles y que podrá salir adelante pese a que no cuente con el concurso cualitativo y cuantitativo inmenso

usted acostumbra a decírnoslos vienen y casan muy mal con las flores y con las calificaciones laudatorias que una persona tan demócrata y tan honrada como ricardo sáenz de ynestrillas les explica a ustedes continuamente cuando dicen que son su partido de cabecera por algo no abandonan el pero fíjese lo que harían de mí o cualquiera
de los miembros de mi grupo parlamentario matute amaitzen joan voy terminando señora presidenta si hubiéramos dicho algo tan divertido

me he divertido mucho con el terrorismo eso lo dijo uno de sus fundadores eskerrik asko matute jauna mistoa upyd

gracias presidenta buenas tardes de nuevo señorías vamos a ver antes no he podido hacer ninguna mención porque se me ha acabado el tiempo

a una cosa que ha comentado este señor matute en relación con la ley corcuera la ley corcuera efectivamente del año mil novecientos noventa y dos es una ley que ustedes también podrán reconocer que

esperemos que la vayan cogiendo pero esa ley no ha tenido ningún problema de hecho hubo un recurso de constitucionalidad y lo único que eltribunal constitucional declaró inconstitucional fue el apartado segundo del artículo veintiuno en relación con unas disposiciones antidroga todo lo demás sigue estando vigente y de hecho lo único que viene pasando que se sigue dignificando sobre todo con este tipo de anteproyectos

hablaba la señora llanos de que tenemos que hacer

se tratan de ser queremos ser más atractivos yo creo que

el adjetivo pero en cualquier caso todo lo que sea atractivo yo se lo acepto se lo acepto pero le voy a decir unas frases que son

democráticas también tienen otro adjetivo que igual se lo diré después

equiparables la libertad y la seguridad no están en la misma proporción

nunca la libertad es prioritaria y la seguridad está en relación

no es por tanto limitando la libertad como se alcanza mayor seguridad no es

ciudadanas como vamos a conseguir mayores cuotas de seguridad ciudadana

como no me voy a poner yo preventiva oiga usted es que me tengo que poner preventiva porque la esquizofrenia política es muy peligrosa es muy peligrosa

y ahora dicen lo que dicen con este anteproyecto de ley me tengo que preocupar y la prevención

no nos gusta el anteproyecto no nos gusta el anteproyecto y por lo tanto como sabemos como funcionan las cosas después solo tenemos dos opciones solo tenemos dos posibilidades que puedan ocurrir

empeorar que es lo que ocurre muchas veces es decir ustedes presentan un anteproyecto y al final lo que sale es una ley mucho peor que el anteproyecto

y pueden decidir perfectamente cuál es el articulado las disposiciones hasta el título de la ley le pueden cambiar lo que quieran y luego hay otra opción que es por la cual nosotros presentamos este tipo o apoyamos este tipo de iniciativas no solo con esta ley sino con la de tasas en fin

y la otra opción es que ustedes las aparcan en el limbo de los justos léase lo que va a pasar

no la retirarán pero dormirá en el trámite parlamentario

lo que va a pasar exactamente porque ya lo ha manifestado el propio ministro

hablando con el consejero de justicia de la comunidad autónoma de aragón que es lo que va a pasar con la ley de demarcación y planta judicial y así sucesivamente y además el refranero español ya se lo he dicho ustedes muchísimas veces es muy sabio y siempre

que es mucho mejor prevenir que curar curar siempre resulta mucho más caro

y por lo tanto nosotros preferimos prevenir

cual es exactamente el quid de la cuestión del asunto que debatimos y es qué es

es un término democrático es un término democrático pero que antes era la seguridad y la seguridad ciudadana es exactamente la ausencia de violencia y de actos delictivos que permita a los ciudadanos ejercer sus libertades

en este caso de la jurisdicción penal y esto lo que hace es

sea muchísimo más grande y los perjuicios a la capacidad de los ciudadanos de quejarse sea

una manifestación también de lo que es exactamente la seguridad ciudadana y

en términos no solamente jurídicos sino también en términos políticos y en términos absolutamente democráticos y es la siguiente la seguridad ciudadana no tiene por sí misma valor constitucional lo tiene tanto que es

y pacífico de los derechos y libertades de la persona consagrados en la constitución todos aquellos intentos de insuflarle vida propia al margen y por encima del sistema de derechos

la esencia de la vida ciudadana en democracia siempre han sido a costa de debilitar tales derechos y libertades y de ponerlos en entredicho cuando la seguridad prevalece sobre la libertad esa prevalencia de la seguridad convertida en ella un valor sino el fundamento

de la historia lo que hace es implicar supresión de derechos y libertades de la persona y la persecución de aquellos
que quieren ejercerlos gallastegui andrea eskerrik asko esa es la cuestión

la señora llanos que lo que se pretende aquí es que este anteproyecto no vea la luz

fue aprobado aquí esta la presentación por el ministerio del interior el veintinueve de noviembre aprobado el texto de presentación aprobado el nuevo texto normativo del anteproyecto de ley para la protección de la seguridad ciudadana por tanto

en marcha en fase de informes y lo que aquí se está diciendo es bueno no solo esta cámara sino todos los grupos y partidos de esta cámara y del congreso es que así no que

no respeta las libertades y derechos fundamentales en cuanto a la competencia bueno que debatir esto en esta cámara es perder el tiempo porque no tenemos competencia

hacer un repaso así a bote de pronto de muchos temas que se debaten aquí y que quizás fueran

yo creo que aquí se ha demostrado que la cámara que el resto de los grupos de la cámara no opina igual que no es una pérdida de tiempo por tanto qué menos

en este sentido y más teniendo en cuenta como hemos acreditado antes que este anteproyecto

creo que es importante que el gobierno sepa cuál es la opinión del órgano soberano de la comunidad autónoma de euskadi esta cámara

la iniciativa esta reforma fue a instancias del grupo

y creo que no fue y de hecho en el debate del once de diciembre el portavoz

por otro motivo por la multirreincidencia no por lo que se ha utilizado luego para hacer este anteproyecto y por último decir que lógicamente

y el principio de proporcionalidad que es un principio jurisprudencialmente consagrado junto con el de idoneidad y necesidad y que para nuestro grupo creemos que
lo que recoge el anteproyecto ninguno de estos tres principios jurisprudencialmente consagrados son objeto de cumplimiento eskerrik asko eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta señor matute yo simplemente lo de patada en la boca leáse la iniciativa porque es que hasta en la traducción en euskera es lo mismo patada en la boca

lo que le he dicho antes no se lo voy a reiterar

es que para mí no es una pérdida de tiempo ya ve que yo salgo en la primera intervención en la segunda y debato yo no digo que se vaya

es que esto quien tiene la competencia es el congreso de los diputados y se lo decía al señor maneiro porque ha hablado de que cómo perdía tiempo el gobierno haciendo esto oiga pues porque es de su competencia

pero es que en esa iniciativa que yo también me la he leído verdad en esa intervención en la diputación permanente el propio

vota en contra de que se retire la ley vota en contra de la moción que ha presentado el partido socialista en lo relativo a que la ley no siguiera el camino

y con esto también le digo a la señora gallastegui yo no sé al final cada uno habla por sus propias experiencias cuando el partido socialista

los informes no les sirven para nada porque les hace caso omiso cuando tiene aportaciones de otros grupos o le presentan enmiendas

hace cambalaches para que se rechacen las enmiendas que presentan por ejemplo el partido popular en la anterior legislatura entonces claro como habla por su propia experiencia como hace caso omiso de los informes del consejo fiscal del consejo general del poder judicial la tramitación de las leyes claro dice no que el anteproyecto se va a quedar tal cual no

positivo este proyecto y en las que no ha dicho que se modificaran con arreglo a las prescripciones que diga el consejo fiscal claro lo que pasa es que ustedes

para nota háganselo mirar pero es que ustedes hablan

pero que les encanta los recursos cuando ustedes están en la oposición cuando ustedes estaban gobernando aquí no había recursos que valiesen pero es que hablan del código penal

el código penal también ha pasado por el consejo de estado también ha pasado y sabe quién ha firmado a favor no votar quién ha firmado con su firma estampada a favor del código penal el señor zapatero y la señora fernández de la vega oiga pues no parece que

no les debe de parecer claro que igual decían vamos a firmar porque como total nosotros no le hacíamos ningún caso pues da lo mismo aunque

cada uno habla señora gallastegui por su propia experiencia

o lo que se había leído es lo que los periódicos decían del anteproyecto porque también se dijo que algunos comisarios europeos estaban en contra del anteproyecto hasta que fue el ministro del interior a explicárselo y entonces ya no estaban

que al partido popular que al gobierno del partido popular nos tratan vamos fenomenal en todas las ocasiones

pues tiene una idea pelín tergiversada de lo que realmente es

uno aquí de verdad no deja de pasmarse

toda la vida diciendo que no hay que penalizar que hay que sacar las conductas del código penal que el código penal tiene que ser la última ratio el último recurso que se tiene que utilizar

hombre y aquí lo que se dice es que cómo que se sacan las cosas del código penal para que sean infracciones administrativas que menuda vergüenza es eso de verdad

ahora vivir para ver con lo cual si se sacan del código penal pero siguen siendo conductas antijurídicas

que es lo que se hace las penas que aquí se han dicho

pero es más por ejemplo la no comunicación de una manifestación que antes era una infracción grave ahora pasa a ser una infracción leve

todo verdad y luego es cierto que hay nuevas conductas que aparecen

tipos porque hay nuevas conductas que aparecen cuando se hizo en el año mil novecientos noventa y dos por ejemplo los escraches

no existían no existían con lo cual ahora ha habido que regularlo o prefieren ustedes que los metamos directamente en el código penal y todos a la cárcel prefieren eso

es lo que están diciendo y el derecho de manifestación

del violento que quien quiera hacer una manifestación pacíica pueda hacerla

reventada por los cuatro que no quieren que haya esa manifestación legítima eso es lo que se trata que sepa el que quiere ir a reventar una manifestación

manifestando su opinión en la calle y nosotros somos los primeros que así lo defendemos

eso eso va a tener una sanción esa es la mejor manera

gracias presidenta y buenas tardes ya a todos en el último punto del orden del día en primer lugar agradecer a las

el debate porque realmente después del trabajo que han realizado durante tanto tiempo creo que podrán celebrar el resultado de la votación en esta proposición no de ley como saben este es un tema que no nace en esta legislatura ha sido debatido

pero es verdad que la proposición no de ley que debatimos hoy nace originariamente al menos de esta forma de la preocupación y la movilización de unos padres

que trabajan en primer lugar porque se cumpla la legalidad vigente porque se cumplan las recomendaciones europeas y esperan que se desarrolle una legislación específica en euskadi

en lo que tiene que ver con la contaminación electromagnética a partir de las actuaciones

los socialistas decidimos presentar esta iniciativa la problemática de la ikastola ibaiondo es conocida ya por todos en esta cámara y además de en vitoria en bilbao ahora también hay un centro educativo que presenta la misma problemática y que trabaja de forma conjunta con la ampa de ibaiondo

ante un problema concreto que desde la política puede y debemos solucionar debemos buscar un equilibrio entre la salud y el interés público pero no debemos permitir que la salud

porque aunque podríamos afirmar como se han afirmado ya

científicos catedráticos que no existen evidencias científicas las dudas son razonables para tantos científicos y catedráticos que habían afirmado lo contrario por lo tanto debemos apostar por ese principio de precaución que es el demandado por la sociedad los niveles de radiación que pueden emitirse están tasados

la normativa vigente a nivel estatal fija unos límites de seguridad y las mediciones

es cierto que es un tema muy científico y muy complejo de explicar pero por otra parte todos sabemos

y hasta ahora la pelota caía del tejado de uno al tejado del otro y aquí nadie quería

por lo tanto los socialistas entendemos que la proposición no de ley que presentamos tenía dos puntos fundamentales aunque entendíamos que en todos ellos

por un lado exigimos la elaboración de una legislación específica por parte del gobierno central es fundamental la modificación del real decreto de ley de desarrollo reglamentario la ley general de comunicaciones

de las personas frente a la contaminación electromagnética además

que sería necesaria la elaboración y desarrollo de la ley además de un plan nacional de investigación sobre los efectos de la contaminación electromagnética

y para los socialistas el mayor logro del acuerdo que vamos a votar hoy aquí es la necesidad de aprobar una normativa autonómica que regule las infraestructuras de radiocomunicaciones con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud de las personas el gobierno vasco también tiene su competencia en el tema y no debiera hacer dejación de ella y parece que no lo va a hacer y mucho menos viniendo de un gobierno nacionalista cuyo tema fundamental en su ideario es la reclamación de competencias porque también es competencia del gobierno vasco el incorporar los criterios establecidos en la normativa

y a juicio de los socialistas el tema de ibaiondo se ha incendiado y probablemente si la sociedad no hubiera ejercicio la presión que ha ejercido sobre la administración quizás hoy el logro sería menor

por lo tanto la proposición no de ley de los socialistas vascos podría resumirse de la siguiente forma

preocupación e incertidumbre entre los padres de los alumnos de un colegio

actuaciones políticas han tenido diferentes derivadas se han pronunciado

se ha pronunciado el ararteko se ha pronunciado el síndico y nos hemos pronunciado todos los grupos políticos que estamos hoy en esta cámara

y evitar la aparición de otros de este tipo porque como hemos dicho al principio

los socialistas desde luego apoyamos el acceso de todos los ciudadanos a las nuevas tecnologías

pero hoy por hoy contamos con un marco normativo concreto a nivel estatal como hemos dicho antes existe la ley general de telecomunicaciones y un real decreto que merece ser actualizado

y cataluña castilla la mancha castilla y león y navarra tiene una normativa autonómica más restrictiva por lo tanto

a nivel municipal parece según los últimos datos según el ministerio de sanidad y consumo

por lo tanto parece que la preocupación ciudadana por parte de las administraciones empieza a tener respuesta aunque es justo decir que viene ya de largo pero lo que está claro es que la normativa estatal ha resultado ser escasa euskadi debe dotarse de una normativa propia

y el ayuntamiento de vitoria debe asumir sus propias competencias es verdad que las campañas de sensibilización e información están bien

pero las campañas únicamente no dan solución a los problemas como he dicho antes cada uno debe asumir las responsabilidades que tiene y ser consecuente con las competencias que en cada administración se tiene pero en cualquier caso lo más importante de hoy es que esta enmienda transaccional

un acuerdo que al comienzo de este debate hace ya unos meses desde luego a esta

euskadi cumplirá con su responsabilidad asumiendo sus competencias que hacen posible solucionar un problema concreto y evitar que surjan otros a futuro desde europa

por último decir que esta es una de esas proposiciones no de ley

demuestran que la política es el instrumento para solucionar los problemas y por supuesto terminar diciendo que

abramos los ojos más de lo que intentamos hacer las fuerzas políticas y han sido capaces de que este problema

a todos hoy a la mañana cuando entraba en este parlamento me ha pasado

muchas mañanas de los jueves había una concentración ahí fuera en la parada del tranvía en esta ocasión una concentración distinta unos padres que además para hacerse más notorios

con unas prendas que se utilizan desafortunadamente cuando existen radiaciones nucleares y que nos recuerdan más a las películas que a la realidad pero no obstante una forma llamativa

uno de esos padres me ha preguntado a ver qué votáis hoy y después de las diferentes

creo que debemos decirles lo que vamos a votar

diferentes formas de ver las cosas diferentes perspectivas pero un mismo problema y vamos a votar juntos todos para resolver una situación compleja por tanto me gustaría entender esta proposición no de ley y la transacción que se va a aprobar

evitar la confusión que existe sobre este asunto y entender que existe también un diagnóstico claro a día de hoy en este momento con la presencia del ampa que también por supuesto saludo en nombre del grupo popular y a raíz del posicionamiento en el parlamento europeo

pero no por ello deja de generar sino alarma preocupación yo me pregunto si existe alguna posición de los padres cualquier padre o cualquier madre que tenga un hijo en esa ikastola

o que lo tenga en cualquier centro cuando alguien le dice como se ha dicho en esta ocasión que existe un riesgo para la salud de los niños

la evidente preocupación y tienen también la necesidad de encontrar respuestas y no vale con las respuestas que han obtenido a día de hoy no valen con las respuestas

que si los científicos dicen que la ley sea justa estamos hablando del corazón estamos hablando

cuando ese debate está presente por tanto está claro

y podemos en mayor o menor grado entender hasta qué punto esa preocupación esa alarma son razonables lo hemos visto en el parlamento lo hemos visto en el ayuntamiento de vitoria lo hemos visto en la calle por tanto hay una cuestión

es necesario regular más y es necesario regularlo mejor y acorde a los nuevos tiempos porque hay que dar las garantías y la seguridad a todo el mundo

el marco de cuál es la manera de medir la manera de actuar la franja en la que las operadoras pueden actuar que son

los propios vecinos comunidades de vecinos en este caso un hotel las propiedades que tienen que entender

pero y sobre todo además también un mensaje

de cuál es el marco que garantiza la seguridad la salud de los ciudadanos en este caso y con más razón todavía de los niños

bien quiero poner de manifiesto en este momento la buena voluntad que yo personalmente he podido apreciar en todas las partes

naturalmente en las instituciones pero también es necesario entender que se ha hecho una labor positiva quiero reconocer y lo voy a hacer a continuación

y además en cuanto a estar a la altura de las circunstancias atendiendo

le reconozco la buena voluntad en todo caso es evidente que

ha resultado insuficiente y por tanto la oportunidad sin duda

parece desde luego así nos consta se aprobará por unanimidad por qué porque los padres y las madres de la ikastola de ibaiondo y toda la ciudadanía en general hemos estado

desde la buena voluntad de los diferentes departamentos escuchando mensajes completamente contradictorios por un lado hemos escuchado supuestamente al departamento competente

es la referencia dejar por escrito plasmado que las radiaciones que existen en la ikastola de ibaiondo no suponen un perjuicio para la salud de nadie eso

dicho lo ha dicho el consejero y lo ha dejado por escrito de ahí que ponía en énfasis su valentía política pero también es verdad

y también con la misma buena voluntad no se entienda de esto una posición crítica desde el departamento de educación se han permitido situaciones como que

las aulas de los niños para que esos niños no reciban radiaciones es un mensaje de la misma administración que supone un claro mensaje de dicotómico una clara un mensaje que es difícil de entender por un lado osakidetza diciendo por escrito no hay riesgo por otro lado educación

se vinilen las aulas para proteger a los niños se ha llegado a decir que se freían como a huevos

es necesario por tanto entender que hay una situación no resuelta buena voluntad en educación sí

de la delegada de educación una funcionaria del ayuntamiento de vitoria pero también

de sanidad y de todas las administraciones también del ayuntamiento de la ciudad pero todo eso se ha mostrado insuficiente y por tanto este momento es un momento crucial y yo creo que es un momento muy impositivo lo decía la señora rojo y lo comparto con ella

para dar una solución y además una solución conjunta en cualquier otra administración ahora podremos hacer referencia a este compromiso que hoy alcanzamos

el gobierno de españa regule regule mejor para que también lo haga el gobierno vasco

una regulación clara una regulación nítida que garantice seguridad jurídica y establezca un marco concreto de lo que se debe hacer de cómo se debe operar y para mí eso es lo más importante que también evite un problema social la tensión vecinal y esa posición de duda

y siente qué está pasando con mi hijo y ante esa duda siempre es normal

como las que hemos conocido me parece que ese

y me parece que hoy el parlamento vasco ante una situación que es evidente

va a dar una respuesta conjunta una respuesta
y una respuesta responsable lo va a hacer por unanimidad a mí me parece un ejemplo ojalá que haya más veces como la de hoy muchas gracias eskerrik asko

dutela porque señor maroto no es o no se puede decir que las ondas electromagnéticas que los campos electromagnéticos no son perjudiciales para la salud ese está superado en el dos mil uno cuando entró en vigor un real decreto a nivel estatal que establecía zonas sensibles y grupos sensibles se estaba reconociendo desde el momento que hay zonas sensibles y grupos sensibles el perjuicio hacia la salud

de los campos electromagnéticos desde el momento en que existe una directiva desde el año dos mil trece a nivel europeo una directiva sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores

de campos electromagnéticos se está reconociendo ya en la legislación europea que hay riesgo para la salud el debate no está en que no sean perjudiciales para la salud sino a qué nivel

y en qué tipos de personas o en qué grupos de personas ahí está el debate por lo tanto no es un debate de corazón o de sentimientos es un debate de cabeza es un debate de traer al ámbito político y a las instituciones lo que científicamente ya está quedando evidenciado no es un debate de sentimientos

parte de dar las gracias por el acuerdo que hemos alcanzado sí que

creo que hay que situar claramente el

porque es cierto que ahora mismo todos nosotros todas las personas que están ahora mismo aquí estamos emitiendo ondas electromagnéticas y no son de los móviles son ondas electromagnéticas infrarrojas que tienen una potencia una energía mucho mayor

y no nos olvidemos que todavía hay otras ondas electromagnéticas con mucha más energía que estas ondas infrarrojas que es la luz visible

nosotros actualmente estamos consiguiendo ya desde generaciones que esta especie humana

que la conseguimos a través de esa famosa onda electromagnética es un poco para que situemos el problema y un detalle también muy importante de cara también

otra característica de estas ondas electromagnéticas es que si ustedes solamente con que se separen dos metros de su compañero van a recibir una cuarta parte de la energía que si estarían

y si se separan tres metros van a conseguir

inversamente proporcional a la distancia al cuadrado algo tan sencillo como que la distancia que nos separemos del foco de emisión de esa onda electromagnética

vamos por ir acortando en este acuerdo quién es el que

lógicamente no es el consejo de europa el consejo de europa hace una recomendación

pero son cuarenta y siete estados que lo que hacen es recomendaciones

quien legisla en la unión europea es el consejo de la unión europea el parlamento europeo y la comisión de la unión europea en qué organismos se basan los legisladores de la unión europea para certificar la evidencia científica en tres organismos sobre todo la organización mundial de la salud

y el comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados

en mayo del dos mil once por el principio de precaución ha clasificado a los campos de radiofrecuencia a estas ondas electromagnéticas de radiofrecuencia como posible carcinógenos y los ha clasificado en el grupo bib es el mismo grupo en el que están clasificado el café

porque hace unos efectos similares en cultivos celulares

lo que facilitan es que haya mucho más iones de calcio en el interior de la célula aparte de otra serie de acciones que hace el calcio

en esta célula humana lo que hace es favorecer unas proteínas

y entenderán por eso lo de los infrarrojos que estamos emitiendo y la luz visible que tiene mucha más energía son defensas

hay un principio y es posible y hay ese principio de precaución que la organización mundial de la salud

en el dos mil once pero también qué hace la organización mundial de la salud y el veinte de septiembre del dos mil trece también nos dice que los estudios realizados hasta la fecha no indican que la exposición ambiental a los campos de radiofrecuencia como los emitidos por las estaciones base

tenemos esa recomendación de mil novecientos noventa y nueve hay un segundo informe en el dos mil ocho hay una última directiva que ya nos la ha indicado el señor maeztu la del dos mil trece que como la tienen es sobre las disposiciones mínimas de salud

los campos electromagnéticos es decir la unión europea va trabajando y la siguiente reunión que tiene la unión europea tenemos

el veintisiete y veintiocho de marzo lo que es la comisión de la unión europea

va a hacer una audiencia pública isiltasuna mesedez de la nueva opinión del comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados sobre los efectos en la salud y los campos electromagnéticos

en la formulación de las políticas es decir dentro de un mes veremos a ese comité científico cuál es la evidencia científica que tenemos ahora mismo

es que no queramos escuchar lo que queremos oír bien pero qué ha dicho también la unión europea la unión europea también ha dicho que los estados son soberanos

puede reducir esas potencias de emisión y eso es algo que es lo que le pedimos

es decir usted tiene ese derecho y lo puede ejercitar referente al punto dos a las competencias que tiene

hay dos comunidades autónomas que han intentado y que lo han hecho han legislado sobre este tema también es cierto

aprender de por dónde van las sentencias del tribunal constitucional y qué está diciendo la sentencia del tribunal constitucional

y los de las comunidades autónomas que son de carácter horizontal como es protección del medio ambiente el tema sanitario y por último sobre todo lo que es la exposición a los campos electromagnéticos que pueden tener una incidencia sobre la salud y que exigen medidas de protección sanitaria en especial para aquellos colectivos que se consideran más sensibles bien qué dice la sentencia

hicieron la ley en el dos mil uno dice

comunidad estado ese tipo de fórmulas son especialmente necesarias en

con las que se consiga optimizar el ejercicio de ambas competencias más

el tribunal ha firmado que la decisión final corresponderá al titular de la competencia prevalente el estado sin que el estado pueda verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia aunque también sea exclusiva de una comunidad autónoma más es constitucionalmente legitimo que el estado regule desde una concesión unitaria dada la unidad intrínseca del fenómeno la utilización del dominio público radioeléctrico y proceda a una ordenación conjunta de todas las variantes de telecomunicación

de radiofrecuencias y potencias para cada uno de los usos en definitiva podemos legislar en la comunidad autónoma vasca sí pero

eso sí que se puede hacer más un poco por hacer alusión a los comentarios yo también le voy a decir señor maroto que yo tampoco dudo

porque cuando vieron esta resolución en el año dos mil once todo esto los ayuntamientos tienen claramente perfectamente dónde está su planeamiento

población sensible ya sea guarderías ya sea colegios y como hemos visto solamente con que nos separemos el doble cómo estamos consiguiendo que la potencia se reduzca que no se hayan puesto unas distancias mínimas de seguridad y no tendríamos ahora el problema de los treinta metros

pero yo también creo en la buena voluntad de los ayuntamientos pero eso también está ahí eskerrik asko eskerrik asko carro jauna

únicamente para decir que estoy de acuerdo con la transaccional que los diferentes grupos han conseguido acordar creo que se ha hecho un buen trabajo de diálogo entre los diferentes grupos y por lo tanto quiero felicitarles felicitarles especialmente a los padres y las madres de la ikastola ibaiondo

y creo que gracias a ellos se ha conseguido el acuerdo unánime y el voto favorable de todos los grupos a esta iniciativa

sí gracias presidenta desde el escaño si me lo permite únicamente para decir que en este parlamento somos muy asiduos a firmar iniciativas por unanimidad o por un amplio consenso y llegar a la tribuna e intentar incendiar el debate entonces a mí me parece que en un tema tan serio como este que ha tenido la repercusión social

más bien provocado por un colectivo ciudadano concreto yo le querría preguntar al señor carro que después de escuchar la parte técnica que esa sí la he escuchado y

yo le quisiera preguntar a usted si usted cree el gobierno del partido nacionalista vasco que es su partido

porque claro usted ha firmado un acuerdo en el que hemos pedido al gobierno vasco el desarrollo y elaboración de una ley en caso de que el gobierno de españa no la haga a lo que ha añadido

porque es verdad que el ayuntamiento de vitoria podía haber hecho cosas que quizás no hizo

en este tema ha mirado a otro lado hasta que no ha tenido la presión social encima

hace lo que dice el señor maroto pero por otra parte desde la consejería de educación

para el apantallamiento de las aulas con mayor riesgo por lo tanto haciendo que los padres adelanten el dinero para algo que un departamento dice que no hay ningún problema y que el otro dice que quizás pongamos medidas que no sabemos bien si puede suceder algo o no por lo tanto la medida transaccional es muy clara ley estatal

ley autonómica estudios mapas y campañas de sensibilización

y el punto más importante para quienes hemos formado parte de esa reunión era el compromiso del gobierno vasco

autonómica sabemos las competencias que tiene el estado en cuanto a las emisiones pero usted sabe las competencias que tiene el gobierno vasco y el gobierno vasco estaba presente y consciente en la sociedad vasca cuando el tema de ibaiondo crecía y crecía

a las preocupaciones ciudadanas porque todos hemos formado parte de esos debates y aquí no pasaba nada

entonces de su discurso hemos entendido la parte científica bien

en algunas cosas que ha dicho también le digo propio de mi desconocimiento e ignorancia de todo no se puede saber en esta vida

quiero que usted me diga si usted cree que el gobierno vasco va a cumplir con lo que dice obviando lo de que españa tiene que hacerlo qué opina el gobierno si usted cree que lo va a hacer

en este parlamento vasco todos sabemos que las proposiciones no de ley son eso proposiciones no de ley por lo tanto no de obligado cumplimiento sino que la cámara hace recomendaciones al gobierno

vienen cargadas de presiones sociales y del trabajo de colectivos de la sociedad civil pues algunos partido políticos tienden a firmar determinados acuerdos para quitarse

porque no es solo el caso de las antenas que espero que no pero ha ocurrido en otras ocasiones que cuando venimos de la mano de las plataformas somos capaces de firmar muchas cosas pero cuando llegamos al gobierno vasco a lakua y allí hay que empezar a gestionar parece que se nos olvidan los acuerdos y quedan en esos cajones que llevan y llevan acuerdos que nunca llegan a cumplirse por lo tanto espero que el acuerdo que se ha llegado hoy aquí

nos merecemos la verdad el esfuerzo que ha hecho cada uno de los grupos por dejar pelos en la gatera porque todo el mundo ha dejado pelos en la gatera y hemos añadido cosas para poder entrar todos espero que no sea una tomadura de pelo

se ponga mañana mismo a trabajar en ese proyecto de ley que cree que solucionaría el problema de las ondas electromagnéticas

el cariño que le tengo no daría crédito a su última intervención

la intervención y no sé si es fruto de que está muy próxima a los corporativos en este caso a los señores parlamentarios que tenía a su lado la están radiando viva pero creo que ha sido usted la que ha incendiado yo

y el sabor de boca tiene que ser el adecuado yo creo que un buen sabor de boca

es ese trabajo se ha hecho un trabajo hoy a la mañana entre las formaciones políticas importantes

un amplísimo consenso el que se suma el parlamentario número setenta y cinco me parece que ese esfuerzo

y lo he apreciado también en el señor maeztu y en usted y también incluso en el señor

pero me parece que lo oportuno después de alcanzar ese acuerdo es dar la oportunidad al gobierno a que cumpla con lo que ha dicho y yo creo que el señor carro en representación de su grupo ha querido dejar manifiestamente clara una cuestión que es la cuestión

desde el principio y que también hemos trasladado desde el ayuntamiento de vitoria muchas veces

hace falta un marco más exacto más completo y más riguroso y naturalmente ese marco se puede dar en los diferentes

el gobierno vasco las ordenanzas y reglamentos municipales en su caso de las diputaciones estamos en esa nunca mejor dicho onda señora rojo pero

después de firmar hoy a la mañana ese acuerdo dar la oportunidad de que se cumpla yo estoy convencido de que será así

una cuestión yo decía yo lo he vivido en primera persona en este caso en el ayuntamiento de vitoria los hemos recibido en el pleno y le puedo asegurar no se lo aseguro porque usted lo ha comprobado al igual que yo en la misma intensidad los padres y madres hablan

desde el interior pensando con la cabeza en qué es lo mejor para sus hijos y para sus hijas y es evidente que el actual marco dejaba muchas dudas y también es evidente y no ha sido en ningún caso ningún reproche a ninguno de los departamentos que se daban un mensaje completamente contradictorio

han estado obrando de forma profesional y con buena voluntad pero es imposible de entender

de la ikastola de ibaiondo de cualquier otro punto de la ciudad o de cualquier otro punto del país vasco

un departamento autoriza consciente comparte y es coprotagonista con panelar vinilar las aulas para proteger a los niños

esto es lo que ha pasado y tener y se lo voy a leer para que quede constancia

otro consejero diciendo con la misma profesionalidad lo siguiente por cierto yo no sé si hay consejeros

que dicen esto y lo ponen por escrito por eso lo quiero poner en valor en el caso del señor darpón se lo leo es un documento mandado a mi correo electrónico

en la dirección de salud pública se estima que según las mediciones realizada la exposición de los menores del centro escolar de ibaiondo ha sido muy muy poco importante asimilable a la exposición en entornos con wifi y abundancia de aparatos eléctricos podríamos tener alguna duda y añade por tanto no cabe esperar una afección de la salud de los alumnos del centro escolar exclusivamente por razón de las antenas situadas

que es donde como conocen ustedes se hallan las antenas que afectan a este caso esto es lo que se dice se dice con la cabeza porque hay mucha gente preocupada con el corazón y con la cabeza que no creo que este sentido haya matices

perfectamente yo me quedo como decía con el buen sabor de boca

un excelente ejemplo ojalá como decía antes haya muchas cosas

dejándose no sé si algún pelo desde luego bastantes cuestiones

para que lo cumpla y yo estoy convencido de que además por el control parlamentario que este parlamento ejerce sobre el propio gobierno que así va a ser también lo digo no sé si el señor carro los conoce yo sí y otros muchos parlamentarios también

se ha movido mucho y lo va a seguir haciendo independientemente de esta proposición no de ley vamos a estar muy vigilantes de que el acuerdo que hoy estamos aprobando se cumpla se cumplan todos sus términos porque es un buen acuerdo y además dice en positivo y mucho
de quienes estamos firmando muchas gracias eskerrik asko maroto jaunak

a un acuerdo en este tema no era cuestión de ponerse

y decir soy el que más defiendo

que están en este tema o no era cuestión de decir todo lo contrario soy totalmente escéptico

en nada de lo que se ha escrito sobre este tema se ha hecho un esfuerzo cada uno se ha dejado algunas cosas en esa negociación nosotros y nosotras teníamos claro cuál era nuestra petición queríamos venir aquí que hoy

la petición al gobierno vasco a sabiendas desde el año dos mil uno el gobierno estatal no está dispuesto a cambiar el real decreto del año dos mil uno a pesar

de las resoluciones del parlamento europeo a pesar de la resolución del consejo de europa no está dispuesto a cambiar la normativa estatal a que hiciéramos uso de las competencias transversales que tenemos en materia medioambiental y en materia de

para desarrollar un ámbito legislativo propio en esta materia creemos que está reconocido en ese texto

pero en aras al buen rollismo tampoco todo es permisible no es permisible señor carro decir frases que como no escuchamos lo que queremos oír alguien pone en duda que

que los campos electromagnéticos son cancerígenos

yo no lo quiero oír el problema es que antes de que oigamos eso a ver si somos capaces

el riesgo de las personas a esos campos electromagnéticos

y lo que pedíamos que se hiciera porque el principio al ara que está reconocido

en la transaccional que hemos firmado un principio que viene a decir tan bajo como sea razonablemente posible es eso

que por qué seguimos manteniendo valores de cuatrocientos cincuenta

cuando se asegura la cobertura y se asegura el funcionamiento de la telefonía móvil a cero coma uno

a lo que queríamos llegar en el día de hoy y luego nos ha venido usted a leer también lo que dice la sentencia del tribunal constitucional es posible que si hacemos una normativa propia según

términos la hagamos tengamos un recurso ya sea del propio estado o de las compañías de telefonía móvil pero mientras tanto lo que tenemos es ciudadanos y ciudadanas que tienen que recurrir a la justicia

a defender su derecho a la salud yo sé lo que van a defender las operadoras de telefonía móvil tienen todo su derecho una operadora

que cuando a final de año presenta las cuentas en el registro mercantil le sean positivas eso es lo que quiere

toda legitimidad pero también sé que un ciudadano cuando nos pide que regulemos esta materia

qué es lo que queremos defender a las operadoras o a la ciudadanía y tenemos esa posibilidad y tenemos competencias y títulos competenciales para hacerlo y sí que me llama la atención oír lo de hagámoslo en cooperación con el estado la misma cooperación

en el copago farmacéutico sanitario unos cuantos leyes reales decretos que tenemos recurridos también en el tribunal constitucional

y un representante del partido nacionalista vasco nos dice que en este tema tenemos que buscar la cooperación suena un poco extraño a estas alturas de la película

porque se pasan la cooperación por

por lo tanto simplemente creo que lo que está escrito queda escrito creo que está

y espero que seamos consecuentes todos y cada uno de los grupos políticos con lo que hemos firmado en esta transaccional eskerrik asko maeztu jauna

del tribunal constitucional porque es el estado el que recurre dejemos a las operadoras en paz

y lo que quiero es que quede todo perfectamente claro encima de la mesa cómo está la situación hoy en día

hacemos la ley nosotros solitos tenemos el recurso del tribunal constitucional y nos tiramos diez años hasta que la sentencia esté

saber en qué territorio estamos jugando en qué territorio estamos jugando en que la sentencia del tribunal constitucional está diciendo que hay dos competencias

pónganse de acuerdo y eso es lo que vamos a intentar porque si no nos ponemos de acuerdo lo que estos señores que al final que es lo que quieren es que les baje la potencia

y quién tiene la potencia quién tiene quién decide ya lo hemos leído en la jurisprudencia eso es telecomunicaciones del estado y eso es

entonces para que queden las cosas bien claras y el gobierno vasco ahí estará

con rigor bien esto fue en el dos mil once cuando llegó esa famosa recomendación

a estas radiofrecuencias la competencia habrá sido la misma en el dos mil doce que ahora en el dos mil catorce

por qué no hizo una ley rápidamente y se acabó el problema pues una de dos

a ver dónde nos metemos luego un poco de sensatez también señora rojo

pero ojo que es que ustedes son unos alumnos aventajados en este caso de conocer qué hace el tribunal constitucional o no porque vamos a ver yo esta semana cuando leo aquí

y conociendo su largo historial del cupo al estado

de lo que sáqueme también todo lo que gastamos del ejercito español

cómo tienen descontado ustedes eso y qué es lo que me encuentro no es que hacen hasta créditos ampliables y hasta de crédito para pagar las cantidades consignadas para el pago del cupo del estado todo

y entonces les paraliza la administración pero claro la administración de gipuzkoa no se puede paralizar el gobierno vasco sí o la solución de estos señores sí que se puede paralizar y estamos diez años peleando con la potencia luego

porque luego encima es que no solamente se saben la lección sino que son alumnos aventajados ojo a todos los ayuntamientos de gipuzkoa qué les han dicho

no quiero ver a uno que se me salte del déficit del estado la ley orgánica a cumplirla y el que no lo haga no le apruebo los presupuestos

por qué porque son un alumno aventajado en esto de saber lo de las sentencias

pues con estos igual a estos señores claridad y transparencia

la conservación de la biodiversidad es responsabilidad de todas las personas empresas entidades administraciones es además una responsabilidad

no puede basar su bienestar en la destrucción del capital natural que es patrimonio común de todas las personas tanto de las que habitamos en el planeta en el presente como de las que lo han habitado y de las que lo habitarán el fututo

surgen de una mirada positiva y compartida acerca de la relación entre la sociedad vasca y la biodiversidad y están encaminados a alcanzar un escenario concreto

agentes sectoriales promotores y profesionales perciben la biodiversidad como un patrimonio común fuente de riqueza para la sociedad que contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas hori guztia dela eta

en un plan de viabilidad con rigor seriedad y participación de los principales afectados los y las socias trabajadoras dicho plan se ha presentado con detalle a mil doscientos gobierno vasco diputaciones forales de bizkaia y gipuzkoa

entendiendo que cada día que pasa sin tomarse una decisión en torno al plan de viabilidad presentado por los socios trabajadores aumentan las dificultades para lograr

insta a mil doscientos a tomar en consideración y dar cauce de desarrollo

este pueda ser puesto en marcha a la mayor brevedad posible eta lau acuerda dar traslado de esta decisión a las instituciones implicadas administradores concursales y autoridades judiciales competentes para que tenga conocimiento de la misma